en la pregunta que me formula es evidente que euskadi tiene ante sí un reto demográfico

son precisamente las personas jóvenes parte de la solución a esa necesidad demográfica como garantía poblacional y como futuro sustento social y económico del país

para esta situación de necesidad de relevo generacional que ya vivimos este gobierno promueve políticas transversales dirigidas a apoyar a nuestra juventud en su formación en su acceso al empleo y en su emancipación social esa emancipación

para el empleo y por tanto la formación es determinante a pesar de que euskadi cuenta con una tasa de abandono escolar del siete por ciento de las más bajas de europa hemos de tener presente que algunos jóvenes en euskadi por diferentes causas

siendo conscientes de esa realidad hemos diseñado un programa nuevo que les ofrece una oportunidad para formarse y acceder a un empleo

aprobado por tanto una convocatoria de subvenciones para la realización de formativas orientadas a este colectivo con esta iniciativa

de personas jóvenes desempleadas que ahora tienen una baja cualificación se trata de animarles acompañarles y de participar en un proceso que va a suponer mucho para ellos

socio personales y técnico profesionales y con estas nuevas competencias se favorece

de estas personas jóvenes además la iniciativa prevé que consigan certificados de profesionalidad de nivel dos la convocatoria está dirigía con carácter exclusivo al colectivo de jóvenes de baja cualificación

se centra en trece itinerarios formativos y hemos habilitado doscientos veintiuno plazas

cada uno de estos itinerarios está compuesto por dos bloques formativos de unas novecientos horas y otro de novecientos cincuenta horas y cuenta con las siguientes acciones en primer lugar formación previa en los certificados de profesionalidad

en segundo lugar de expedición de certificados de profesionalidad de nivel uno módulos formativos parciales acreditables formación en centros de trabajo y formación básica

que tienen acreditada la formación y están inscritas en los registros autonómicos o estatal de entidades de formación las principales materias que se van a impartir tienen que ver con los campos de madera carpintería

entre dieciséis y veinticinco años y que estén inscritas en lanbide esta formación se estructura en una organización flexible y adaptada a las circunstancias personales y a los diferentes niveles de cada joven y estas acciones formativas servirán de impulso y apoyo de este colectivo joven
desempleado y vulnerable hacía una vida independiente y satisfactoria eskerrik asko

nuevo proyecto empresarial eta hau da hau da kontua nuevo proyecto empresarial esan nola artikulatu dezakegu parte hartze publikoa en un nuevo proyecto empresarial baina hemen

cabría el análisis de diversos apoyos en el sentido descrito para un nuevo proyecto sucesor de la actividad actual cómo que cabría el análisis

gure atea irekita dago martínez jauna estos veinticuatro meses euskadi ha avanzado en positivo ha crecido la economía y el empleo estos son nuestros objetivos prioritarios

hablan de cierta desaceleración en nuestro entorno y plantean unidad de acción y realismo ustedes lo han aplicado en el estado y en navarra lo han aplicado allí han evitado propuestas extraparlamentarias y además

aquí por el contrario han preferido seguir con un testimonio y un testimonialismo estéril

en otros lugares y restar aquí es su decisión y tendrán que explicarla no con el planteamiento que ha hecho usted hoy aquí la decisión del gobierno en los próximos meses

y la prestación de los servicios esenciales a la ciudadanía eskerrik asko

ohartarazteko prieto jauna zurea da hitza presidenta señorías consejero de comercio turismo
y consumo creo que hoy es un día propicio para hablar de consumo hoy que se inicia con el viernes negro esta campaña estúpida en el mundo para

y que aquí que nos hacemos una vez más eco también de estas campañas impostadas de los estados unidos vamos a tener estamos teniendo ya un bombardeo comercial

innecesario y que sin embargo por contraposición dentro de una semana hoy se están peleando muchas gentes por entrar por correr y por adquirir determinados productos que probablemente no necesitan y dentro de una semana miles de voluntarios del banco de alimentos en los comercios de alimentación donde hay muchos ciudadanos que no pueden entrar porque no tienen capacidad de comprar esperando la solidaridad de las personas que quieran donar alimentos para poder seguir alimentándose

ante estas dos contraposiciones que si las ilustramos un poquito más con lo que está ocurriendo a nivel mundial nos encontramos que según naciones unidas en el año dos mil cincuenta en el mundo habrá nueve mil seiscientos millónes de ciudadanos en la actualidad hay siete mil trescientos

de ciudadanos al nivel de cómo se consume hoy se necesitarán tres planetas por lo tanto estamos ante un problema ahora mismo irresoluble y ante una situación que probablemente hay que colocarla en orden de importancia con otros problemas como el cambio climático como la paz como el reparto

en fin como problemas que son ya problemas de la humanidad por lo tanto el consumo en la relación de los poderes públicos con el consumo se ha convertido en un problema de primer orden y usted tiene entre sus competencias

kontsumobide el instituto que fue creado en dos mil siete que se puso en marcha en dos mil once en el gobierno que presidió el lehendakari

y desde entonces se vienen haciendo trabajos importantes para que el consumo sea responsable sea proporcional

y efectivamente los poderes públicos tienen deben están obligados a intervenir porque en el fondo estamos hablando de un problema que afecta directamente

en el campo de la igualdad mientras unos acceden a consumo de manera irresponsable otros

a la solidaridad o a las políticas públicas ante todo este desaguisado kontsumobide

una mayor importancia desde el punto de vista político cobra una relevancia

el consumo sea seguro sea transparente sea acorde a lo que se anuncia sea proporcional y respetuoso entre lo que se dice que se vende y lo que finalmente adquiere el consumidor y en ese sentido kontsumobide tiene un plan anual de campañas de inspección de control que como

a estas alturas se han realizado por lo tanto es oportuno que en estas circunstancias

cuál es ese trabajo de kontsumobide y sobre todo se quede con esta

y es que desde los poderes públicos hay que hacer una política social para que el consumo además de ser responsable de ser seguro y todo ese tipo de cosas
vaya avanzando hacia una igualdad y pueda satisfacer las necesidades que nos vienen que son muchas y para las que todavía no estamos preparados eskerrik asko

empezaré diciendo que comparto muchas de las reflexiones que ha lanzado

que afecta al mundo que construimos y que por lo tanto debe ser ocupación de la administración pública también y de la gestión pública de consumo no solamente en términos de protección de derechos

en qué mundo construimos tanto por ejemplo como cuestiones también muy importantes como el cambio climático pero en efecto

un plan de campañas de inspección y control y son acciones que refuerzan la labor cotidiana a lo largo del año del instituto vasco de consumo

el motivo de elegir para tales campañas determinados temas o determinados sectores viene determinado por un criterio de oportunidad según

o la repercusión que en colectivos sensibles como por ejemplo personas mayores o la infancia

el periodo en el que se decide las campañas existe en este ejercicio kontxumobide está llevando a cabo entre otras campañas de inspección sobre los siguientes asuntos en primer lugar hemos realizado una acción destinada al control del etiquetado y seguridad en los disfraces destinados a menores una campaña que se ha reforzado en determinadas fechas y que ha dado lugar como resultado la inmovilización

han sido decomisados por el servicio de inspección en tanto que podían haber supuesto un riesgo para la seguridad de niños y niñas en segundo lugar este año hemos prestado especial atención a la comercialización de servicios online kontsumobide ha desarrollado una campaña sobre el control de cláusulas abusivas en los créditos formalizados

en tercer lugar se ha impulsado asimismo una campaña de control de cartas y precios de menú en hostelería con doscientos veintiuno inspecciones en empresas de hostelería

la campaña de control de las cláusulas abusivas en los contratos de residencias para la tercera edad se realizaron dieciséis inspecciones que han dado como resultado quince expedientes a otros tantos centros residenciales de la tercera edad los expedientes han derivado en sanciones económicas de hasta cuatro mil quinientos euros

de eliminar dichas cláusulas los hechos considerados abusivos han sido entre otros la revisión de precios a un índice no vinculado a la variación del ipc o que los precios de la estancia se aplicaran en función de la evaluación clínica del residente la legislación como sabe impide que se puedan aplicar más costes en función de un mayor o menor grado de dependencia también hemos detectado sancionado y corregido condiciones en los contratos que limitaban

que excluían o limitaban la responsabilidad del centro asistencial pero como le digo estas son solo algunas de las campañas realizadas pero desde luego ha habido bastantes más muchas más como la referidas por ejemplo al etiquetado y composición del pan de molde la trazabilidad

en la venta de vehículos usados para finalizar quiero destacar que ya estamos trabajando en la planificación de las campañas que realizaremos en el próximo ejercicio

un mayor número de quejas o reclamaciones o sobre aquellos asuntos en los que recibimos requerimientos concretos por parte de otras instituciones o asociaciones de consumidores

desde la unión europea siempre con el objetivo de velar por la efectiva protección de los derechos de las personas consumidoras y que no vean sus intereses lesionados eskerrik asko

señoras y señores consejeros señorías señor lehendakari cómo valora sus dos primeros años de legislatura eskerrik asko

corto escaso balance el que parece que usted quiere hacer y yo le he puesto esta pregunta como le hago

su balance efectivamente es escaso le voy a dar un par de datos porque el tiempo va pasando

y se nos han ido ya dos años a usted el tiempo se le está pasando volando nos dijo que iba a traer fíjese estos dos años diecinueve proyectos de ley ha traído cinco ha aprobado dos vamos a ser generosos voy a poner tres diez quince por ciento cumplimiento de sus compromisos no está atendiendo a los compromisos que tenía con esta cámara incapacidad para hacer reformas y cuál es el resultado y cuál es la valoración dos años después pues que vive usted como sánchez de las rentas de rajoy

fue bien que hubo un acuerdo en la renovación del concierto económico que se pactaron las inversiones para la llegada de la alta velocidad a euskadi que se pactaron otras inversiones importantes aquí que vive usted de las reformas económicas que hizo también aquel gobierno de rajoy y que por tanto simplemente con estar quieto pues ya ve que efectivamente el número de parados va descendiendo en la comunidad autónoma pero no por mérito del gobierno ni porque hayan ustedes emprendido ninguna reforma económica

que el tiempo va pasando hay falta de actividad y que usted tendría que apretar mucho estos dos años que quedan y yo se lo he dicho siempre hemos apoyado dos presupuestos y por tanto hemos garantizado la estabilidad del gobierno para que usted pueda hacer luego no hace porque se dedica más a administrar que a gobernar gobernar es intentar cambiar algunas cosas al menos las que funcionan mal yo que sé la economía la educación

a administrar y le dije y se lo reitero siempre para todo ese trabajo que son incapaces de hacer puede contar con nosotros estamos dispuestos siempre a negociar y a negociar sus leyes sus reformas para sacarlas adelante pero no estamos dispuestos a ser el tonto útil de sus acuerdos con la izquierda abertzale eso no lo vamos a ser y no podemos

ponderada equilibrada sensata de buen trata pero si es que me gusta usted pero fíjese que

de ibarretxe se decía que era tan ponderado que era un tecnócrata artur mas también todos fueron acometidos de un padecimiento que se llama el síndrome de moisés

se ven en una deriva y piensan que pueden conducir al pueblo vasco a la tierra prometida y ahí están los de bildu que le miran desde la orilla y le dicen cruza cruza el mar rojo ya verás cómo se abren las aguas y sabe lo que ocurre

yo creo que a usted eso no le va a pasar pero yo se lo tengo que decir encarecidamente estamos viendo signos

ha subido al sinaí ya a por las bases de la ley y las tiene aquí y él sí que también está diciendo

de la constitución de la ley también de la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca yo le he dado la oportunidad de que ustedes

se lo digo sinceramente esta gente lo que quiere

nada mareando la perdiz no le van a aprobar nada serio o en el mejor de los casos lo que desea es que se ahogue

hemos avanzado en la respuesta a los retos y los objetivos de país que nos hemos planteado euskadi crece crece la inversión crecen las exportaciones crecen las personas que nos visitan en euskadi están creciendo la afiliación a la seguridad social y el empleo

lo puede comprobar y contrastar a diario en lo que es la ejecución de todos los compromisos de todas las acciones de todas las iniciativas verá que tenemos sí

usted tiene dos alternativas contribuir a sumar y a avanzar en base a este programa o sumarse a quienes ustedes mismos califican de populistas demagogos oportunistas

tampoco convirtamos este foro como el club de la comedia señor alonso mire puedo entender la crítica

o a iniciativas y acciones concretas del gobierno y lo tomo como un acicate para mejorar y así lo tomo ahora bien la valoración global merece una apreciación más positiva está usted en el empeño de anunciar el fin del mundo en euskadi

mayor equilibrio entre demanda y oferta en cualificación de sus trabajadores mayor tasa de supervivencia de los nuevos negocios menor tasa de abandono escolar

y tenemos la sanidad pública mejor valorada creo que esto no es como consecuencia de la inercia

todo es fruto de un esfuerzo colectivo en el que también participamos las instituciones creo tenemos dos años por delante súmese a sumar

la puerta del diálogo y el acuerdo está siempre abierta para todos los grupos parlamentarios también para el suyo señor alonso abierta para aportar abierta para invertir abierta para construir
y abierta para sumar eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

lealtad constitucional gogoratu behar dugu

ppko ministro baten ahotik entzun genuela el cumplimiento del estatuto de gernika es anticonstitucional

de verdad es un hito es un despropósito

a nuestra disposición para impedir que el estado apruebe leyes o reglamentos para desactivar o para suprimir nuestras propias decisiones galdera hori da

que hemos compartido y aprobado en esta cámara no entro en la gestión de las iniciativas que desarrolla

que el gobierno vasco va a trabajar denodadamente por lograr ese objetivo el calendario y el plan de trabajo es una reclamación al gobierno español pero estamos dispuestos

no solo a colaborar sino a elaborar una propuesta que pueda ser presentada al gobierno español con el objetivo de que sea tomada en consideración y contribuya al cumplimiento íntegro del estatuto de gernika cumplimiento íntegro significa cumplir la ley

incluidas todas las transferencias que están aprobadas en el estatuto que es ley la primera obligación del gobierno español es cumplir la ley en su integridad

lo que reclama a los demás ha citado usted en la primera intervención el planteamiento

no se corresponde no se corresponde ni con el programa de gobierno que afecta a dos partidos políticos

como un referente de atención sanitaria que goza del respaldo de la sociedad

por eso señor lehendakari mi grupo puso en la agenda política de este país las ope dopadas de osakidetza porque pensábamos y pensamos

unas prácticas cuyo origen se remonta a los tiempos del franquismo y a las que se han sometido sin oponerse durante todos estos años en palabras del doctor jaca arrizabalaga médico director general del instituto

hace más de cinco meses que elkarrekin podemos daba a conocer un acta de manifestaciones en el que acertábamos quienes superaban la ope de su especialidad con amplia ventaja bastaba

y tenían el encargo de diseñar las pruebas para ir sobre seguro nadie nos había dado ningún tipo de información privilegiada solo queríamos poner sobre la mesa lo que era vox populi sin embargo

ha elaborado y ahora en manos de la fiscalía sabemos que el treinta de mayo cuarenta y ocho horas

el servicio vasco de salud desecho investigar los exámenes de cardiológica especialidad en la que desde el veinticuatro

fue alertada de que había sospechas antes incluso de la celebración de los exámenes de hecho un mes antes de la celebración del examen señor lehendakari

corriente en este tipo de exámenes el doctor loma osorio miembro del tribunal de cardiología tuvo el encargo por parte del instituto vasco de administración publica ivap

el examen teórico de manera aparentemente confidencial y planteó que en la segunda prueba la práctica se repitiese la fórmula para que el tribunal se liberase

anteriores y que habían derivado en chivatazos para beneficiar a aspirantes muy concretos días después

leo textualmente lamento decir que tengo razones fundadas

tiene intención de compartir el material generado para la segunda prueba a una filtración selectiva quedaban unas tres semanas para el examen y no se actuó no se hizo nada señor lehendakari y mes y medio después

por qué si no hay nada de qué preocuparse está la fiscalía investigando pidiendo incluso

el señor consejero defendió la limpieza del procedimiento a pesar de que la propia administración había decidido suspender la adjudicación de las plazas en cuatro categorías

cardiología y cirugía plástica ante el escándalo de las ope dopadas

incluso no pudo evitar el y tu más para echar balones fuera señor lehendakari

su consejero el señor darpón no ha estado a la altura nosotras queremos que osakidetza

y mirando al futuro no creemos que su consejero sea quien deba dirigir el departamento del que nuestro sistema de salud depende no ha sido responsable

y más concretamente a tres médicos anestesistas roberto

que tuvieron la valentía de sacar a la luz el clientelismo de las ope de osakidetza y posteriormente a las personas opositoras a las que se les obligaba de nuevo a repetir la prueba y de nuevo sin ningún tipo y sobre todo sin que se dirimiese ningún tipo de responsabilidad la fecha para esos exámenes ha sido pospuesta sin que sepamos el motivo

de limpiar osakidetza de prácticas clientelares y tal y como venimos denunciando desde el primer día

dar carpetazo y querer tapar cualquier siembra de duda sobre su gestión y sobre cualquier elemento que demostrase el fraude el camino se hace andando

en la composición de un tribunal para garantizar el acceso a una candidata a la jefatura de angiología y cirugía vascular del hospital universitario de álava la fiscalía de álava ha abierto diligencias de investigación ante la posible existencia de irregularidades en el reciente nombramiento

según una denuncia interna el candidato que resultó elegido entre los tres que se presentaron al concurso pudo haber presentado documentación falsa para acreditar los requisitos profesionales exigidos pese a que fiscalía sí ve indicios su consejero a pregunta de esta parlamentaria

en las últimas semanas hemos conocido el nombramiento de la nueva directora de emergencias y mujer

sin experiencia en ese ámbito y obviando candidatos experiencia en emergencias esto es excelencia señor lehendakari

en junio ya advertimos a la señora múgica y al señor soto que estaban en jaque

no es suficiente la responsabilidad política toda

ese es el movimiento que ustedes han realizado pero no nos sirve

o por el bien común de su partido en todo caso señor lehendakari cómo piensa reconducir el departamento de salud tras la salida de la señora múgica hecho que constata

zera bilatu da sortutako arazoa ez dezala politikoki baldintzatu eusko jaurlaritza usted decía en la justificación también de su interpelación

y el objetivo señora macazaga se ha expresado con absoluta claridad su voluntad es que

no condicione políticamente al gobierno vasco y esta es la razón de una decisión personal

ha aceptado una decisión que sería justo reconocer ante pone el interés público y contribuye a reconducir la situación eso sí manteniendo el mismo grado de compromiso y responsabilidad que osakidetza ha demostrado

desde el primer momento y seguirá demostrando hasta que la oferta pública de empleo culmine

la situación se reconduce con responsabilidad y con compromiso y vamos a finalizar la investigación y vamos a mejorar el sistema de cara al futuro bai

horrela egiten jarraituko dugu y es cierto sí ha anunciado en estos últimos días en los medios de comunicación que la fiscalía ha llamado a la señora maría jesús múgica para que declare como testigo como testigo

tal y como ha hecho hasta la fecha porque la fiscalía ha recibido

esta cuestión de forma completa y lo ha hecho

motu propio no hemos ocultado los problemas hemos tomado todas las medidas con absoluta transparencia hemos solicitado disculpas a las personas que participan en el proceso selectivo hemos atendido todos los requerimientos recibidos y hemos ofrecido toda la información

y así lo vamos a seguir haciendo ahora nos encontramos ante una oportunidad para crear un nuevo modelo de oferta pública de empleo que se adecue a las necesidades presentes y futuras la propuesta se ha presentado aquí y la mano está tendida para trabajar conjuntamente

señora macazaga durante treinta y cinco años osakidetza ha ganado un merecido prestigio social hoy osakidetza es un bien común de la sociedad vasca reforzar

mejorando cada día sin duda pero también reconociendo el servicio público de calidad que ofrece y transmitiendo confianza confianza la señora múgica insisto ha actuado de manera profesional desde el primer al último día ha culminado su trabajo presentando ante este parlamento toda la información

las propuestas de mejora de cara al futuro su dimisión se produce en ese momento una vez presentadas también todas las propuestas de mejora

en el inicio de una nueva etapa para afrontar los retos de futuro la propia maría jesés múgica ha entendido que los cambios estructurales que se plantean

requieren de la máxima confianza respaldo y respeto por parte de todas y de todos el gobierno vasco agradece su compromiso con esta nueva etapa que se inicia

señor lehendakari en este mismo pleno el señor darpón dijo como ustedes

ni se lo adelanto señora ubera y señora macazaga la última que vamos a convocar esto a mí me preocupa señor lehendakari en boca del doctor este fraude se viene produciendo desde el franquismo con lo cual

también dijo que el proceso necesita aclaración por el conjunto de los opositores y por el buen nombre del sistema público de salud no se nos ha aclarado nada

si se demuestra alguna irregularidad se han demostrado irregularidades de hecho

y existe el cambio de un modelo que se supone que todavía queremos conocer la causa

ha hecho ningún tipo de buscar responsables ante esta situación señor lehendakari

nos parece un posible avance siempre y cuando antes se depuren responsabilidades de quiénes hayan podido cooperar o por inacción en el fraude de la ope también nos parece adecuado traer un nuevo modelo de ope pero hay un paso previo y es que como he dicho no se conoce

qué le falla a este actual modelo para tener que cambiar a uno nuevo nosotros le preguntamos en comisión ante la negativa

que nos diga cuál es el motivo por el que hay que cambiar el modelo actual qué falla no lo sabemos se dan pasos en una dirección

porque desconocemos la causa por la que se decide ir por ese camino se nos está ocultando una y otra vez las causas por las que se actúa así desde el primer momento se ha elaborado por parte del consejero el señor darpón una serie de escusas

o de mantos para ocultar su nefasta gestión en esta crisis y sus políticas que amparan un modelo clientelar del aquí no pasa nada a no hay pruebas

tras el cual se quiso que mirásemos a otro lado y pensáramos que todo quedaba resuelto con la repetición de las pruebas

de nuevo a parte de las personas opositoras en el último mes

que propone un cambio de modelo sin que sepamos cuál es el problema a solventar señor lehendakari de nuevo estamos en esas la dimisión de la señora múgica cuyas causas no las conocemos ha sido otro manto que pretendía que todo quedase resuelto porque si la señora múgica ha dimitido para no condicionar políticamente al gobierno quien

no hay mejor publicidad para osakidetza señor lehendakari y además gratuita

y nos tendrá como oposición precisamente para eso para controlar a su gobierno y recordarle la responsabilidad que tiene con toda la ciudadanía no podemos estar gastando recursos en marketing para limpiar la mala gestión del máximo responsable del departamento de salud

de atención sanitaria y que goce del respaldo de la sociedad lehendakari jauna berriro ere eskatzen dizugu darpón sailburuaren kargu uztea cese usted al señor darpón y profesionales grupos políticos y toda la sociedad en general podremos mirar al futuro mila esker

en esta tribuna lo que me sorprende es que no escuche en las sesiones de comisión

personas especialistas que vienen a explicar cuáles son las razones de la propuesta señora macazaga yo no sé si usted tiene interés en escucharme pero en todo caso le reitero que hemos abierto ocho expedientes informativos los tribunales señora macazaga han decidido repetir las pruebas

continuar el proceso en las otras ochenta y tres categorías hemos solicitado disculpas a las noventa y seis mil personas que han participado en la oferta pública de empleo especialmente a las trescientos dieciséis afectadas

adquirido el compromiso de culminar la ope con plenas garantías de igualdad de oportunidades también en las tres categorías pendientes

hemos informado a los tribunales comisión de seguimiento grupos parlamentarios y ararteko hemos enviado los expedientes informativos a la fiscalía reitero por iniciativa propia

ha colaborado con la fiscalía en todo momento y lo ha hecho con maría jesús múgica y lo va a seguir haciendo

respetando la presunción de inocencia de todas las personas las que han tomado parte en este proceso desde el primero hasta el último tribunal desde el primero hasta el último profesional presunción de inocencia desde el primero

las explicaciones han sido públicas han sido constantes el estudio psicométrico se presentó aquí las propuestas de mejora se han presentado aquí

ni la valora señora macazaga a usted todo le parece igual o parece darle igual y es capaz de defender una cosa y su contraria

la paralización completa de toda la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete y ahora resulta que se opone a que se repitan los cinco exámenes que tres tribunales han decidido repetir usted pide que se pare todo y luego pretende que no se cambie nada a usted ninguna explicación le vale y a su vez

continúa ofreciendo una atención de calidad continúa mejorando su servicio público mejorando su servicio público

con dedicación y trabajo de miles de profesionales salidos de esas ope que usted denuncia este prestigio es fruto también de una gestión de una organización

agradecemos a todos los gobiernos y departamentos anteriores entonces y ahora

mucho más que una oferta pública de empleo mucho más y personalmente

y en mi caso especialmente con un agradecimiento al departamento anterior en la anterior legislatura y al departamento actual dirigido por el consejero

durante treinta y cinco años incluida la trayectoria dedicación trabajo y generosidad de maría jesús múgica desde el primero al último día me siento

y profesional por encima de una oferta pública de empleo el pasado viernes culminó

mi agradecimiento a todas las personas que han contribuido a que el servicio sanitario público vasco

y sea el mejor valorado de todas las comunidades eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako zortzigarren puntua galdera

señor lehendakari en su condición de lehendakari de este país obviamente yo quiero preguntarle por un hecho

informativa y política también social del debate en euskadi y es en relación

al resultado que ha tenido esta plataforma en la convocatoria que hizo recientemente en determinados municipios de gipuzkoa especialmente en la capital en donostia a pesar de los

por parte de algunos miembros de su gobierno por alentar este tipo de iniciativas a pesar de los ímprobos esfuerzos de miembros notables de su partido y de esta cámara su portavoz el señor egibar

esta iniciativa y desde luego todo el mundo ha convenido que el fracaso es notable y ha sido más que evidente en su convocatoria en su celebración en donostia tal es así que también han pedido ustedes una reflexión es decir han alentado

un procedimiento no ha funcionado y piden una reflexión lo que yo quiero saber es que reflexión hace usted y si también hace autocrítica en relación

singularmente de su gobierno que es lo que más le compete pero qué reflexión hace usted con respecto

miembros de mi gobierno creo que usted está desfasado está desfasado ya en el tiempo y en todo caso si quiere traerlo aquí ahora yo creo que ya se dieron las explicaciones en su momento pertinentes señor sémper seamos también honestos en el planteamiento en relación a los miembros del gobierno eusko jaurlaritzak beti errespetatu egin du herritarrek sustatutako ekimen sozial hori

yo por aclarar también una cosa del inicio nadie cuestiona al menos yo no lo hago el respeto que me merecen todo tipo de iniciativas ciudadanas y esta tampoco lo que estoy interpelándole es sobre el hecho político en sí

y también cabe recordar porque a veces alguno se les olvida hay también quienes no somos independentistas en euskadi lo que parece un hecho también objetivo es que todos podíamos coincidir en que no existe una pulsión

a favor del independentismo en euskadi no existe una pulsión que arrastre masas en las calles vascas que protagonice el debate social y político

hipotética independencia de euskadi lo que sí existe es una voluntad de alentarlo de prender ese movimiento

insisto es evidente y es obvio que bildu está en esa posición política de intentar alentarlo y de intentar despertarlo y no es menos obvio que hay miembros destacados de su gobierno y también de su partido insisto también su jefe el

ese movimiento porque participa en él porque lo avalan y porque

que tenga efectos prácticos también es verdad que ustedes el partido nacionalista vasco

en las bases aprobadas en esta cámara concretamente por la ponencia de autogobierno

en un mismo objetivo yo lo que le quiero decir señor lehendakari es que sería ventajoso

de esta convocatoria en donostia por ejemplo para

jugando con fuego y es verdad que el movimiento social y el movimiento ciudadano es muy legítimo pero lo que debe de primar es la institucionalidad

usted está haciendo un mal negocio porque están por un lado alentando ese movimiento ciudadano por otro lado le están dando carta de naturaleza en las bases aprobadas

hay incertidumbre en cuanto a las cuentas públicas y no parece que este usted siendo capaz de encontrar más apoyos aparte del silente del partido socialista más allá de bildu y lo que es peor es que puede ser un mal negocio para la sociedad vasca de enfrentamiento

de carácter social y ciudadano la cuestión es relevante desde el punto de vista cualitativo yo tengo un alto sentido institucional

que las instituciones públicas son la representación genuina de la voluntad popular creo en la participación y escucha activa de la sociedad como parte de nuestra responsabilidad institucional no creo en alternativas de sustitución a las instituciones públicas

usted insiste en poner el foco en este caso también en el dato de la participación lo ha hecho en la primera intervención para hablar de fracaso y me pregunto

si lo que le parece determinante es la cantidad el problema tiene fácil solución acordemos una consulta legal y pactada gestionada institucionalmente y salimos de dudas de un modo irreprochablemente democrático si esta vía tampoco le valiera cuál es la solución escuchamos o no escuchamos esta es la cuestión y yo creo que hay que escuchar y además saber interpretar señor sémper en euskadi conviven sí sentimientos de pertenencia nacional y aspiraciones políticas

diferentes distintas y nuestra tarea creo que es encontrar puntos de encuentro democráticos para la convivencia dentro de la pluralidad

es plantear una propuesta institucional que sea acordada pactada refrendada por la sociedad vasca y respetada

lehendakari jauna sailburuak compañeros compañeras parlamentarias

puesto que fue convocado mediante convocatoria publicada en el boletín oficial del país vasco en dicha convocatoria se determinaban los requisitos para participar en

una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos de las personas presentadas se procedió al análisis de las candidaturas a fin de seleccionar la persona que a criterio de la dirección general del ente público consideró más adecuada para el puesto

voy a volver a repetirlo el puesto al que se interesa es un puesto directivo de una organización

la propuesta que hemos presentado en la comisión de salud

pudo acudir aquel día es para mejorar la oferta pública de empleo y las ofertas públicas de empleo presente y futuras y estamos dispuestos a compartirla con todos los grupos como así se ha hecho no estamos hablando de cargos públicos

los puestos definidos como cargos públicos que son los que están recogidos en el catálogo de cargos públicos de euskadi

del gobierno vasco son de convocatoria pública en las de sus requisitos y se resuelven

usted si yo no recuerdo mal al igual que yo en alguna ocasión ha tenido un puesto libre de asignación y probablemente entenderá que las razones

y tener experiencia sino que hay una fundamental que es confianza en este caso concreto se realizó la convocatoria pública a través del boletín oficial del país vasco el dieciséis de julio

comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de cada una de ellas

de sus competencias resolvió la misma y comprenderá usted que para la persona que se ha presentado la valoración no es

que no es ningún cargo directivo porque muchas de las personas

por su experiencia sus requisitos y la confianza que ellas generan no por si tiene un primo

helburuei y por qué digo esto porque imagínese que el gobierno vasco

en la futura isla del talento y excelencia en zorrozaurre el edificio papelera imagínese que el alcalde de esa villa

para cederle el espacio gratuitamente repito ceder dicho espacio gratuitamente

el referente a obras y conservación se recogiera expresamente que el mantenimiento la conservación y el ornato correrá a cuenta de la empresa

comunicación no solo la cesión gratuita como he dicho del espacio sino también el regalo de quinientos mil euros de medio millón de euros para condicionar

y de esa manera el convenio suscrito por el propio ayuntamiento imagínese que además este anuncio lo hiciera sin que dicha escuela privada

la autorización al departamento de educación para impartir estudios superiores de diseño en bilbao e imagínese que mientras tanto el alcalde del pnv presentará sus presupuestos para bilbao y lo que iban a ser quinientos mil euros en un principio de repente se multiplique y sean un millón doscientos mil euros y eso

y funcionamiento por parte del departamento de educación imagínese ahora que uno de los socios fundadores de dicha escuela de diseño privada en forma de cooperativa y vice presidente del consejo rector

erkoreka jauna realmente este tipo de respuesta tan breve y concisa

no ayuda tampoco a disipar dudas que puede haber entorno a este proyecto de la escuela privada de diseño

en zorrozaurre porque es cierto y usted seguramente me lo dirá en la segunda ronda

el día anterior a acceder al cargo este director deja

también es cierto que hasta este mismo verano no se ha procedido nombrar a su sustituto y es algo que también extraña y a los hechos me remito

y que hay instituciones que están actuando de manera que colisiona con principios como transparencia igualdad de oportunidades y buen gobierno y es que además este

que debe dar la autorización creó esta empresa privada de diseño mientras era director de un centro público de formación

asociación de directores de centros públicos y claro vamos sumando cositas y el curriculum de casualidades y practicas dudosas sigue engrosando y le invito a que mire el curriculum que del señor director de planificación urbanización tiene colgado en irekia donde en su carrera profesional tiene

otra pequeña casualidad que nos hace sospechar de ciertas cuestiones y bueno espero en su segunda intervención y ya que el tiempo se me agota para comentar otra serie de cuestiones una actitud un poco más proactiva y resolutiva

defensiva y justificativa porque nosotros téngalo claro que vamos actuar con responsabilidad y en defensa

eginkizun politikoa genero ikuspegitik aztertzen dugulako y eso implica hacer una análisis crítico de absolutamente

o de poner bonitas palabras que no tienen reflejo en el día a día euskal herria aginteek

este es el mandato es su mandato y no lo digo yo lo dice emakunde

un plan interinstitucional de apoyo a las familias que no incorpora la perspectiva de género de manera transversal un plan

foto de la esquinita un plan que tiene mucho que mejorar en materia de igualdad porque va dirigido al fomento de la natalidad aunque ustedes

que usted ha presentado desde la esquinita colocándose en el mismo lugar en el que pone al género pero no solo es el plan de familia

el género tampoco está ni se le espera y además retoma conceptos ampliamente superados como son

es invisibilizar a las mujeres no tiene en consideración cómo la pobreza atraviesa a las mujeres y como no se puede suspender a la rgi a quien deja un empleo un empleo por estar de baja por maternidad y eso lo hace su departamento

ni se implementa la perspectiva de género ni se leen el impacto de las medidas desde esa perspectiva ni hay indicadores específicos el plan de sinhogarismos no tiene rastro de la incorporación de la perspectiva de género

o debería saber al menos que la transversalidad no se impulsa así en el plan de empleo no aparece ni en los objetivos ni en los indicadores si bien usted ha tratado de vender como ha podido

casi dos años llevamos trayendo aquí actuaciones que demuestran sobradamente que su departamento no mira a las mujeres los datos nos avalan el ararteko nos avala

y un altísimo porcentaje de recomendaciones y resoluciones sin resolver baina ez hori bakarrik asteazkenean emakumeen mobilizazio bat egon zen haiek

mujeres de origen magrebí acusando a lanbide de racismo institucional del abandono de las mujeres a las que ustedes dicen considerar un grupo de riesgo

es esta la forma de implementar el género en el plan de convivencia pero no se queda ahí la memoria de presupuestos admiten que casi la mitad de las mujeres que soliciten las ayudas económicas por ser víctimas de violencias machistas se quedarían sin ella

para instar a su gobierno a repensar esas ayudas y ustedes bajo la excusa de modificación de leyes y pactos que no avanzan siguen también sin avanzar

al menos en el discurso les debería ocupar porque parece que una parte importante de estas ayudas se ha quedado sin conceder por cuestiones burocráticas

tengan que ver con las dificultades que generan los propios criterios de acceso y eso es un enfoque aparte de injusticia es un enfoque preocupantemente

preocupantemente injusto pero sobre todo es incoherente con que luego se lleven las manos a la cabeza

eso sí por parte solo de sus parejas o exparejas faltan alternativas reales y específicas y esto no es una opción es una obligación y un

prioritaria y es esto para lo que hoy estamos aquí queremos formular una pregunta

no es una tarea solo de emakunde y entre las materias que aborda su departamento y en realidad todos los de este gobierno este elemento no solo debe ser central sino que debe ser prioritario

baizik eta baldarkeria queremos que nos cuente señora artolazabal cómo va a evitar que el quehacer de las instituciones públicas en euskadi replique en la desigualdad cómo van a evitar que sigan dejándonos en la estacada cómo van a hacer que las mujeres que están sufriendo violencia en el hogar en el ámbito de la pareja o en cualquier otro ámbito se animen a denunciar cómo van a evitar que las empleadas de hogar no se queden en la calle y no cumplan los imposibles requisitos de la rgi

el octavo lugar en el mundo pero a pesar de ese alto grado de desarrollo

estamos todavía lejos de la igualdad real en el último índice de desigualdad entre hombres y mujeres de la unión europea

francia reino unido y bélgica en dos mil diecisiete en euskadi ochenta y nueve empresas y entidades reconocidas como entidades colaboradoras por la igualdad

asumieron el compromiso de avanzar en dicha igualdad cincuenta y siete entidades colaboradoras participan junto con emakunde

de la red bai sarea de entidades y empresas para contar con un espacio de colaboración que multiplique el impacto de los planes de igualdad de las distintas organizaciones la tasa de actividad de las mujeres se sitúa a más de once puntos porcentuales de distancia respecto a la tasa de actividad de los hombres y la tasa de ocupación de las mujeres

al cuarenta y cuatro coma tres es decir diecisiete coma dos punto porcentuales la tasa de trabajo a tiempo parcial está bajando

euskadi registra un cuarenta y cuatro coma nueve por ciento en el segundo trimestre del dos mil dieciocho cinco coma siete puntos menos que en el cuarto trimestre de dos mil diecisiete y ocho coma cuatro puntos menos que en el cuarto trimestre de dos mil dieciséis y la tasa registrada en nuestra comunidad se posiciona por debajo de la tasa del estado pero somos conscientes de la situación de desventaja en la que

y a la hora de desarrollar su carrera profesional es por eso que en la planificación o diseño de las medidas que realizamos

en cuenta la perspectiva de género el gobierno vasco es sensible a la situación de desigualdad

aquí y en toda europa y por ello adopta medidas decisivas

el compromiso con la igualdad del departamento de empleo y políticas sociales y de todo el gobierno vasco es real disponemos de recursos presupuestarios humanos y técnicos para tal fin

que lidera emakunde son casi treinta años trabajando por la igualdad en breve aprobaremos también un nuevo plan de igualdad del departamento de empleo y políticas sociales

treinta y cinco iniciativas destacan para promover la igualdad entre hombres y mujeres de nuestro departamento no debemos olvidar que los presupuestos de cada departamento

y le quiero recordar señora guanche que nosotros dentro del departamento tenemos tres competencias en esta materia una en relación a la ayuda económica de pago único para mujeres víctimas de violencia de género

y por último la gestión integrada de recursos en materia de violencia de género

de asesoramiento información además también concedemos subvenciones a proyectos que luchen para erradicar la violencia contra las mujeres y en dos mil diecisiete

pero también desarrollamos medidas con perspectiva de género en el plan de empleo

en el plan estratégico de servicios sociales por ejemplo se contiene una acción que hemos plasmado en el estudio sobre el acceso al sistema vasco de servicios sociales desde la perspectiva de género

del sistema vasco de servicios sociales pero además también estamos colaborando en la definición y puesta en marcha de un plan interinstitucional que tiene como objetivo disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres en el ámbito laboral nuestro plan de choque contra la brecha salarial contiene

un programa de ayudas a pymes para el diagnostico implementación de medidas para reducir la brecha salarial

un programa piloto de buenas prácticas en empresas para la conciliación corresponsable y una línea de subvenciones específicas para la elaboración de estudios y apoyo a la implementación y a la implantación de programas de conciliación corresponsable en pymes

otra forma de violencia contra las mujeres en la que estamos poniendo el foco es la sufrida por las mujeres sin hogar hasta hace poco estaban invisibilizadas y se incluían dentro de la categoría

no teniendo en cuenta sus necesidades específicas como mujeres son

este domingo el veinticinco de noviembre es el día internacional de la no violencia contra la mujer y es el día mundial de las personas sin hogar en el terreno de la conciliación hemos presentado para el proyecto de presupuestos una medida pionera en el estado los más de diecinueve millónes de euros para la financiación de los permisos a progenitores no gestantes también el nuevo programa para el año dos mil diecinueve incorpora

con más de setecientos mil euros y el millón de euros que se va a destinar para proyectos singulares que generen opciones de empleo para colectivos en desventaja

que ofrecemos oportunidades de empleo a nivel local para colectivos entre los que se encuentran las mujeres evidentemente este departamento está trabajando activamente en contra de la desigualdad

de los diferentes programas en todas las esferas políticas económicas y sociales hemos vivido una decidida incorporación de la mujer al mundo laboral

no ha resultado igual a esta realidad hay que sumarle el hecho de que el envejecimiento de la población aumenta la necesidad de cuidados

políticas en el ámbito de la igualdad la corresponsabilidad en los cuidados la visión positiva de la parentalidad así como la incorporación real y efectiva de la mujer constituyen un elemento fundamental de las políticas que venimos desarrollando en el gobierno para alcanzar
la igualdad real de la sociedad vasca mila esker eskerrik asko

acto de propaganda pero bueno estamos acostumbradas

que por ejemplo hay un diez por ciento de diferencia entre el acceso al empleo de las mujeres entre euskadi y suecia o dinamarca

bueno de eso ya hablamos me habla usted de competencias y a mí lo que me sale decirle es que esto

esto va de transversalizar la acción de género porque la igualdad es una tarea y una responsabilidad del conjunto de la ciudadanía y por supuesto del conjunto de los poderes públicos también de su departamento aunque solo tenga esas tres competencias respecto al plan interinstitucional sobre la brecha salarial dos

dos reuniones no tiene además o no se pueden garantizar según sus propias palabras presupuestos concretos en torno a este elemento y luego la verdad es que nos genera una cierta sorpresa ver el grado

de contradicción con el que se habla cuando

cuando se habla de invertir dinero en acabar con la brecha salarial y al mismo tiempo invierten ustedes dinero en ahondar en la brecha salarial este año vemos en los presupuestos

de ayudas económicas que se supone que amplían el presupuesto de su departamento en políticas de igualdad de género las primeras ayudas a la natalidad las políticas de natalidad simplemente aplicadas desde esa óptica siempre siempre siempre perjudican a las mujeres y no tienen nada que ver los deseos y las posibilidades de las personas de ampliar su familia con

elemento que encontramos en estos presupuestos ayudas a la conciliación que emakunde reconoce en su propio informe de impacto de género de los presupuestos que son perversas y ustedes las meten como ayudas para luchar contra la desigualdad entre mujeres y hombres y eso

tercer monto de ayudas económicas en su departamento para luchar contra la desigualdad las ayudas de corresponsabilidad a personas que no hayan disfrutado de la baja maternal

si acaso las llegaremos a ver en otoño su gran titular de este año está inflado y es humo nosotras que desde esta perspectiva cuestionemos el compromiso con la igualdad de su departamento zuen aurrekontuak

eraldatzeko asmorik ez dugu ikusten pero no solo es eso

plantea una serie de elementos aquí en su gran acto de propaganda y se olvida de mencionar por ejemplo que desde el año dos mil diecisiete existe un informe de evaluación del impacto en función del género en la exclusión social y en la pobreza que usted debe tener guardado en un cajón porque

del trabajo de su departamento ni desde luego está contemplado en toda la retahíla de planes que podría haber seguido si hubiera tenido más de diez minutos

su gobierno y ahí tiene un debe tiene un debe histórico con las mujeres porque el género tiene un carácter determinante en la configuración de los itinerarios de exclusión y no vale no vale con un eje especifico señora artolazabal pero no vale tampoco cuestione un valor fundamental en las políticas sociales porque usted es la máxima representante de las políticas sociales de este gobierno y usted ha cuestionado aquí el valor de la equidad

a una mujer con cuatro hijos que solo cumplía la ley usted está cuestionando el valor de la equidad zure gobernuarentzat eta zure sailarentzat berdintasuna eta justizia ez dira

que desde luego no es mi estilo y no tengo no lo suelo hacer

siempre siempre siempre me hace una crítica sin alternativas y usted se cree que es la única defensora de la igualdad y de las políticas sociales de este país y hombre yo creo también los demás hemos hecho hemos venido haciendo y seguiremos haciendo en conjunto con el resto de los agentes e instituciones

claro y que somos conscientes de que tenemos un problema en este país que significa que todavía las mujeres y los hombres no somos iguales y que por tanto tenemos que implementar políticas

eliminar esa situación de desigualdad somos conscientes como le digo de que los indicadores más relevantes en relación al empleo y la situación desde la perspectiva de

nunca me he escondido y además también le he comentado todas las iniciativas que desde nuestro departamento y el resto del gobierno

aunque también estamos viendo que se está dando un crecimiento sostenido del volumen de los contratos de que la mujer se está incorporando al conjunto del empleo también somos conscientes de que mayor número de contratos que se están firmando tienen que ver con contratos temporales en la que la mujer es uno de las mayores perjudicadas pero esto señora

una forma de contrato en el que la mujer sufre de una forma mucho más de una forma

la parcialidad también se da en mayor número en los contratos firmados por las mujeres y también

que con las medidas y las políticas que estamos llevando adelante entendemos que tenemos que paliar ustedes también tienen responsabilidades en otras partes y todavía yo no he visto ninguna iniciativa que se aplicando en este sentido pero sí que también estamos aplicando el principio de equidad de género en el plan estratégico de empleo y sí que lo aplicamos en los diferentes planes que desde

implementando promovemos incentivos para que se apoye la generación de empleo para que se favorezca específicamente la inserción laboral en colectivos con situación de vulnerabilidad femeninos en este caso porque tenemos mayores dificultades de inserción también desde lanbide se está adecuando

obviando los estereotipos ligados al género porque señora guanche nosotros en lanbide no discriminamos a nadie no discriminamos a nadie también me da un poco de pena que les haga gracia lo que les estamos contando porque yo creo que es una cuestión muy seria y que desde luego a mí no me produce ninguna risa también incentivamos la presencia de las mujeres en los sectores en los que encuentran

apoyamos la mejora en la calidad del empleo de las mujeres reducimos las tasas o estamos impulsando la reducción de las tasas de temporalidad y parcialidad pero

y pongo el acento en la palabra corresponsable porque si la conciliación es corresponsable no avanzamos hacia la igualdad y estamos en una reflexión

las ayudas que tenemos son ayudas que han ayudado a las familias en este país y sí que es verdad que tenemos que hacer esa reflexión en la que estamos ahora mismo inmersos para adecuarlos a los nuevos tiempos con ese objetivo de mejorar y de eliminar esas desigualdades

y es una realidad que la sociedad actual tiene una demanda importante en relación a los cuidados a la sensibilización a la parentalidad positiva la corresponsabilidad y a la realización de las actuales ayudas con el objetivo

laboral únicamente para las mujeres yo señora güanche reitero el compromiso que tiene este departamento y todo el gobierno vasco con la igualdad

con recursos presupuestarios humanos y técnicos y somos conscientes de las necesidades y actuamos en consecuencia y es evidente que estamos mejorando le pese a quien le pese ya que la situación de las mujeres en el empleo también está mejorando nos queda mucho por conseguir pero creo
que con las iniciativas que se están implementando iremos avanzando en esta igualdad real mila esker eskerrik asko

ez ditugu ikusten este gobierno anuncia al principio de la legislatura y concretamente una comparecencia sustanciada en la comisión de empleo y política sociales de veintidós

cambios para mejorar el sistema de protección y para mejorar también el sistema vasco de empleo

pero tenemos que decir desde el grupo popular que tras dos años de legislatura

es bastante negativo y no tenemos noticias reales

en lanbide por eso le preguntamos a la señora consejera si es intención de este gobierno implantar este sistema de identificación ya de forma
definitiva e inminente en lanbide eskerrik asko garrido andreak

presidente andrea gracias señora garrido por su interés en este tema ya que me da la oportunidad de poderle informar con detalles sobre cómo estamos avanzando en la implantación de este sistema el gobierno vasco está procediendo a la implantación de la huella digital como mecanismo de identificación para mejorar la gestión de lanbide

tecnológica eficaz y moderna en la que trabajamos con detalle desde el inicio de la legislatura

para ello hemos realizado diversas pruebas necesarias para un adecuado funcionamiento de su tecnología concluida la fase piloto y finalizada la prueba que se ha realizado en diez oficinas de lanbide para marzo de dos mil diecinueve la extensión del servicio la utilización de los datos biométricos en la identificación y prestación de servicios con criterio de voluntariedad se está desarrollando conforme al calendario de implantación previsto cuyas etapas son en principio

entre abril y septiembre del año dos mil dieciocho desarrollamos una fase de prueba

que se va a prorrogar hasta marzo de dos mil diecinueve dado que los ajustes que se han detectado en la puesta en marcha de la aplicación

necesario estabilizar la misma y ha sido hasta fecha de hoy nueve mil cinco personas las que voluntariamente

este sistema nuevo de identificación biométrica a la hora de conceder sus datos pero finalmente ahora a finales de marzo del año dos mil diecinueve se desarrollará la fase de extensión a todas las oficinas de lanbide a las cuarenta y dos oficinas de lanbide

será para todas las personas usuarias de todos los servicios de lanbide y para facilitar las relaciones con la administración resultaba esencial habilitar un sistema simple rápido y seguro de identificación y autenticación así como de firma de la ciudadanía
es lo que hemos hecho para mejorar la gestión de lanbide y la rgi y es en lo que estamos señora garrido eskerrik asko

sí señora consejera lo que pasa es que hay que decirlo que van bastante tarde ustedes pasaron de negar la necesidad de realizar cambios en el sistema de

pasados dos años de legislatura tenemos que decir que el balance deja mucho que desear o que prácticamente no hay balance mejor dicho seis años porque el señor urkullu lleva gobernando en esta comunidad autónoma seis años

como anuncio y como un anuncio muy novedoso la implantación de la huella digital

nosotros sí efectivamente queremos que la huella digital sea un mecanismo efectivo de control y que sirva para mejorar la gestión y la nefasta gestión de las ayudas sociales pero le digo lo que importa es aquí saber cómo está exactamente esta cuestión porque ustedes parece que están

la implantación real y efectiva de la huella digital como medio de identificación en lanbide

para incrementar los controles y avanzar en una buena gestión en lanbide que como le digo falta le hace

en una comparecencia el veintidós de marzo que iban a implantar

para mejorar la gestión del sistema de protección social casi va a hacer dos años y usted nos viene aquí con un balance

que han realizado una fase piloto con unas pruebas y que van a empezar a implantar esta medida en marzo de dos mil diecinueve o sea dos años para que realmente y veremos

de familia que como usted también sabe es una preocupación del partido popular por la falta

con las cosas que afectan a los ciudadanos y a las personas es que esos son los problemas reales de los ciudadanos vascos los ciudadanos vascos están preocupados no ven a lanbide como un servicio de referencia

no van a lanbide porque no lo consideran lanbide un servicio eficaz en la búsqueda del empleo hay un problema también con la cronificación

en el sistema porque lanbide sencillamente no funciona ustedes todavía no han puesto en marcha una reforma integral de lanbide que ponga

y de las personas que reciben ayudas sociales ustedes todavía aquí no han traído porque lo han traído los dos grupos que apoyan al gobierno una reforma de la normativa vigente por lo tanto señora
consejera el balance como le digo deja mucho que desear en esta materia eskerrik asko

sistema biométrico de identificación de las personas no del modelo de lanbide ni de la reforma de lanbide ni de la reforma de la rgi pero bueno yo si quiere

está planteada en este parlamento está en este momento paralizada o está esperando mejores tiempos para poder ser consensuada

va a hacer en relación a la misma y por tanto en cuanto tengamos iremos avanzando en este modelo

entendemos que nosotros a la hora de la implementación del sistema de identificación biométrica es un sistema complejo a la hora de

son cuarenta y dos oficinas un nuevo modelo de atención en el que por razones que todos ustedes conocen ha sido muy cuestionado y ha sido

que nada tenían que ver con la mejora de lanbide sino con otras serie de cuestiones y que desde luego nosotros entendiendo lo que creíamos y creemos realmente en la mejora de lanbide hemos

no es fácil señora garrido dos años no son nada a la hora de implementar un modelo de identificación de este calibre y por tanto yo sí quiero
poner en valor el trabajo que desde lanbide estamos realizando para mejorar la calidad del sistema que hacemos mila esker eskerrik asko

gracias señora presidenta señoras consejeras señor consejero señorías

y como usted bien sabe el asunto de esta interpelación trae cuenta del decreto

en el que el consejo de gobierno de la comunidad autónoma del país vasco aprobó el plan territorial sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y equipamientos comerciales

la superficie máxima para equipamientos comerciales la comisión europea aprobó lo que denominábamos la directiva de servicios en dos mil seis y que tenía como fecha de entrada en vigor

directiva que eliminaba el requisito de prueba económica o justificación económica que se venía exigiendo para la implantación de grandes establecimientos comerciales

en la transposición de esta directiva de servicios y mediante la ley siete barra dos mil ocho de modificación de segunda modificación de la ley de actividad comercial se modificó el régimen jurídico de implantación de los grandes establecimientos comerciales

ley establecer el mandato de revisar el plan territorial sectorial de equipamientos comerciales en el plazo de un año en cualquier caso

entraba en vigor la directiva cosa que no se hizo desde luego durante el año dos mil nueve y sucesivos a nivel estatal se fueron aprobando modificaciones de leyes para ir incorporando el principio de la directiva de servicios de tal manera que este conjunto de normas que vinieron a trasponer la directiva de servicios

de manera no coincidente con el modo y manera que lo había hecho el legislador de nuestra comunidad autónoma o sea esta cámara

establecimientos comerciales debía estar suficientemente motivado y justificado en una norma de rango legislativo la propia ley

requisitos y obligaciones que no se cumplen en el plan territorial sectorial de creación de suelo para

reglamentario tal y como corresponde a la naturaleza jurídica

esto no se corrigió en su momento y derivó en un recurso en dos mil diez ante el acuerdo del ayuntamiento de san sebastián de aprobación definitiva

de san sebastián y de dos mil diez a septiembre de dos mil quince todos conocemos en esta cámara se ha tratado

y que concluye en la sentencia de tres de septiembre de dos mil quince sentencia en la que se viene a decir que el plan territorial sectorial de creación pública de suelo

no tiene rango de ley y que además no justifica suficientemente el cumplimiento de las condiciones de no discriminación necesidad y proporcionalidad y por lo tanto declara nulos el régimen de ordenación establecido en el pts porque comporta una

de carácter reglamentario lo que provoca la desaparición de las limitaciones normativas para el establecimiento periférico de grandes establecimientos comerciales

el modelo de equilibrio comercial que se defendió en esta cámara y que se pretendía alcanzar mediante la modificación de la ley en el año dos mil ocho

a los criterios de ordenación que queremos aplicar para seguir con el objetivo de propiciar un modelo de equilibrio comercial y que además sea coherente con la jurisprudencia reciente del tribunal de justicia de la unión europea que fundamenta las restricciones que por razones de interés general como la protección de medio ambiente y la ordenación del territorio

más reciente el tribunal de justicia de la unión europea ha señalado que la razón de protección del entorno urbano también puede ser un argumento

a los núcleos de población y que puede tener un perfecto encaje en la razones de interés general y señor consejero créame

que compartía con los grupos de la oposición y me refiero a la enmienda de transacción que aprobamos entre el grupo eh bildu y podemos y grupo popular y que ustedes o los grupos que apoyan al gobierno no se sumaron en

y que lo que veníamos a decir que es necesario modificar la ley de actividad comercial porque era lo que daba seguridad jurídica como lo había dicho la sentencia y que posteriormente la modificación vendría la modificación del plan territorial sectorial y

la modificaciones de planes generales que estaban pendientes

por lo tanto señor consejero esto último de los planes generales no lo dijo en comisión lo dijo en la prensa verdad pero la realidad

hoy en noviembre estamos todos en un mismo punto de acuerdo algo que no pudimos no supimos no conseguimos hacerlo en junio

y esto para mi es una muy buena noticia y tenemos que saber

para conseguir el objetivo y el objetivo desde nuestro punto de vista es que en esta legislatura podamos hacer la modificación de la ley y la modificación del pts y ese sería

que apoyan al gobierno lo entiendo para nosotros es básico es básico que trabajemos de la manera más eficaz y más eficiente para conseguir esa modificación que no se nos quede parada por distintos organismos del gobierno y que acabara la legislatura y no hallamos avanzado eso sería un fracaso

que creo que después del tiempo transcurrido esto requiere de agilizar los trámites porque usted señor consejero

allá por la primavera la primavera es de marzo a junio son tres meses a mí me gustaría saber si usted tiene un calendario marcado un plan hecho hay muchas maneras de hacer esa modificación me gustaría saber cuál es su propósito creo que tenemos que ser lo más eficaces

y por lo tanto puesto que estamos en ese consenso de que todos coincidimos en el objetivo cómo

calendario tiene previsto conseguir hacer estas modificaciones que están pendientes porque usted anunciaba que hay unos planes generales que se quedan

y esos planes generales son importantes para los núcleos urbanos esos planes generales además del aspecto de los equipamientos comerciales tienen

para esos centros urbanos para esas ciudades y los pueblos por lo tanto señor consejero creemos

de urgencia porque el tiempo desde el dos mil ocho a día de hoy pues creo que ya es hora diez años y eso nos obliga primero a entendernos que ya lo hemos conseguido y segundo a ser ágiles y eficaces

de nuestro departamento sobre la modificación de la ley de actividad comercial para dar respuesta a la anulación por el tribunal supremo dos mil quince

que imponía limitaciones a la superficie máxima para equipamientos comerciales y tengo que aclararle

proponer una modificación de la ley de actividad comercial sino que lo que vamos a hacer es elaborar una ley nueva específica

comerciales al recibir el texto de su interpelación

con motivo de la presentación de los presupuestos sin embargo he revisado

hablo de regular el asunto mediante ley y de anteproyecto de ley pero sin hacer ninguna referencia en momento alguno a que dicha regulación fuera a realizarse modificación la ley de actividad comercial también debo precisarle

no supone necesariamente un aplazamiento en la regulación de esta materia lo que vamos a hacer es sustituir lo que antes iba a ser un decreto aprobado por el gobierno

yendo a lo sustantivo creo que es conveniente repasar los hechos que han llevado a nuestro departamento y al de turismo comercio y consumo a adoptar este criterio el consejo de gobierno en sesión celebrada el veintidós de marzo del dieciséis

aprobada como usted sabe mediante decreto en diciembre de dos mil cuatro y el cumplimiento de la sentencia del tribunal supremo de tres de septiembre del quince cuando yo entro al gobierno me encuentro con este mandato y

como usted sabe el supremo anuló a instancias de dos empresas del sector las limitaciones a la creación a ampliación de grandes superficies comerciales recogidas en el plan territorial sectorial por considerar que eran contrarias

en la normativa europea conocida como directiva bolkestein en cumplimiento de este acuerdo como le decía nuestro departamento empezó a trabajar en la revisión parcial del pts en lo relativo a los grandes centros comerciales

el avance de esta revisión fue sometido a trámite de audiencia información públicas a todas las administraciones públicas territoriales y personas interesadas

el dieciocho de marzo de este año en este proceso

que de la sentencia del supremo puede y debe interpretarse

es decir que una limitación de derechos recogidos mediante una norma con rango de ley solo puede establecerse con una norma de rango análogo y no por un decreto

y en aras de dotar de la mayor seguridad jurídica a la futura regulación

a la dirección de desarrollo legislativo y control normativo del gobierno vasco y el dictamen que emite el servicio jurídico central concluye

a libre establecimiento de centros comerciales basado en razones medioambientales y de ordenación del territorio requiere de una reserva legar es decir que debe abordarse mediante una ley

competencia determinantes es la de ordenación del territorio

este informe este dictamen de los servicios jurídicos centrales tuve ocasión de informarles en la comisión de hacienda con ocasión de los presupuestos el día siete de este mes y decirles que hemos puesto en marcha la contratación de una asistencia técnica para la elaboración de la futura ley de regulación territorial de los grandes centros comerciales una ley

va a recoger el espíritu los principios y el contenido

por qué no se tomó esta decisión antes ya sabe usted que en estas materias

y hasta ese momento los servicios jurídicos y los técnicos

para dar cobertura legal a las limitaciones que se pretende introducir

valoraron que lo que había que hacer es fundamentar de forma adecuada e incuestionable que dichas restricciones

y se aplicaban por motivos ambientales y de ordenación del territorio debido

no urbanizado el medio rural la movilidad y la red de transporte y no por el ánimo de proteger al comercio

que el tribunal supremo sentenció como incompatible con la directiva

de hecho se interpretaba que había habilitación suficiente en la ley de actividad comercial

dispone lo siguiente para la implantación de grandes establecimientos comerciales

por la que se aprueba definitivamente el plan territorial sectorial de equipamientos comerciales de la comunidad autónoma del país vasco que es el instrumento de ordenación territorial

en el ámbito de la comunidad autónoma incluso

con objeto de adecuarlo la directiva dos mil seis barra ciento veintitrés del parlamento europeo y del consejo

en el mercado interior es decir se consideraba

para regular estas limitaciones en un nuevo plan territorial sectorial aprobado mediante decreto y que lo que

las razones medioambientales y de ordenación del territorio que las motivaban sin embargo al surgir

del pts en el sentido de que quizá no era suficiente una remisión genérica de una ley se ha decidido

en un proyecto de ley especifico porque

es hacer una regulación con plenas garantías cubriendo

que pudiera darse muchas gracias eskerrik asko arriola jauna

señor consejero efectivamente usted según la transcripción de la comparecencia suya dijo que se comprometía a elaborar un anteproyecto de ley que recoja el espíritu de los principios contenidos en el pts

que ya existe se puede conseguir esto sabe han optado ustedes por hacer un proyecto de ley un anteproyecto nuevo

no me ha contestado a lo que yo le he preguntado es su objetivo que en esta legislatura tengamos aprobado el anteproyecto y el pts ese es su objetivo o no

lo peor porque mire la sentencia es muy clara y todos sabíamos que la seguridad jurídica porque lo dije muy claro lo entiendo hasta yo

si lo dice claro nos exige un texto legal no

y eso lo sabe usted lo sabía su departamento y también sus servicios jurídicos del departamento claro que lo saben desde el minuto uno desde septiembre de dos mil quince

y todos sabíamos que esto era una modificación de la ley claro que sí lo sabemos entonces ustedes contratan

qué casualidad que solo la contratan para hacer el avance qué pasa era para tenernos entretenidos dos años señor consejero

a decirnos la verdad pero es que nos está proponiendo haciendo una propuesta para dilatar otros dos años y acabar la legislatura sin aprobar nada

tremendo ante esta situación dejar esto otra vez en el aire señor consejero yo quiero dos cosas un compromiso y ya no le voy a decir que lo haga por modificación de ley o por un anteproyecto nuevo que sea ágil

y un calendario para aprobar estos dos textos en esta legislatura y que acabemos la legislatura con estos deberes hechos porque de lo contrario creo

que están más dinamitando esta iniciativa que es cumplimiento de una sentencia que es cumplimiento

en el aire y señor consejero esto se puede hacer porque si quiere agilidad se puede hacer de muchas maneras lo puede hacer el gobierno si realmente

carne en el asador para conseguir ese objetivo lo pueden hacer los grupos que apoyan al gobierno trayendo un proyecto de ley una proposición de ley y lo hacemos mucho más ágil

puesto que todos coincidimos y si no lo tendremos que hacer como último recurso desde los grupos de la oposición señor consejero creo que merece la pena que le dedique a esto un tiempo corto pero eficaz

pero el objetivo no puede ser otro que el de aprobar la nueva ley o la modificación de ley

por lo tanto señor consejero yo le pido un calendario cuál es su objetivo

pero creo que usted es un aspecto que cuando usted llega sabe que está en el aire y que en estos dos años

que el enfoque la interpretación mire yo creo que usted tiene

que esto también tenían ellos esta interpretación de modificación de la ley encima de la mesa otra cosa es que usted no lo haya elegido como criterio

gracias presidenta señora lópez de ocariz yo no he venido aquí a no decir la verdad

ni a irme por las ramas primero he contado lo que ha ocurrido

que ordena revisar el plan territorial sectorial

determinaciones referente a los grandes centroscomerciales

en el dictamen que hace el gobierno en el que ratifican la necesidad

también tratan cuál sería la fórmula mejor para

esta situación y lo que dicen

esta modificación se hiciera en base a un retoque de la ley de actividad comercial pero no consideran que esta sea la mejor solución una posibilidad sería la de modificar la ley de actividad comercial

y la justificación de las mismas por razones de interés general

sería más adecuado introducir esas limitaciones para la implantación de equipamientos comerciales a través de una ley distinta de la ley de actividad comercial en la medida que las materias

y urbanismo y medio ambiente lo que vienen a decir es que

por lo que resulta procedente que el proyecto de ley se promueva desde el órgano competente en esta materia bueno yo lo que estoy haciendo es

que se me hacen desde los dictámenes jurídicos porque en este asunto vamos a intentar en la medida de lo posible no incurrir en errores del pasado para evitar que puedan prosperar impugnaciones que es el riesgo que tenemos en todo esto hay que justificar muy bien las cosas

del territorio esas justificaciones tienen que tener peso específico para ser creíbles y desde luego para nada se puede justificar en razones de equilibrio comercial entre unos operadores y otros porque si no

para nada el objetivo que podemos nosotros introducir en la modificación de este asunto porque estamos hablando de que

son vigentes ya tenemos la experiencia del pasado y desde luego hay que andar

para que las cosas se hagan con solvencia suficiente para que puedan aguantar los recursos que seguramente

ocurrirán una vez más y yo

el objetivo nuestro objetivo es tener preparado el proyecto de ley tener

hacia mayo del año que viene de forma que se pueda tramitar con todos los informes necesarios y se pueda

hacia finales del próximo año de forma que haya tiempo suficiente

en ley una vez se tramite por esta cámara y una vez que

estaré cumpliendo de alguna forma con esos compromisos y con esos objetivos que

hoy en esta tribuna y a partir de esa presentación en la cámara

también tendrán que trabajar para conseguir que ese proyecto de ley se convierta en una ley y yo creo que aquí desde el punto de vista de lo que son los objetivos hay un consenso importante en esta cámara

a la materia y en cuanto a las cuestiones que debería de recoger ese proyecto de ley pero hay que hacerlo con la suficiente inteligencia para hacer

en este caso mediante ley tenga potencia para

gracias señora presidenta señor becerra hace usted en la justificación de su pregunta y de alguna forma también aquí en esta tribuna en estos momentos

dice que es cuestionable la transmisión de la autorización ambiental concedida en octubre del dieciséis a la empresa biomasa glefaran

y me sorprende porque la voluntad del legislador como se refleja en el artículo nueve de la ley de prevención y control integrado de la contaminación es que las autorizaciones ambientales puedan

desde cero y también decirle

pero que no me consta para nada que sea cuestionable y en cuanto a las irregularidades en las licencias de actividad a las que alude sabe que los permisos con concede la administración local los ayuntamientos

no al departamento de medio ambiente por lo tanto

debo responderle que no es intención de nuestro departamento anular la autorización ambiental concedida

sino garantizar que su actividad se realiza en todo momento conforme a las condiciones fijadas
y con garantías plenas para la salud de la población y del entorno natural muchas gracias eskerrik asko

cuando las incidencias y molestias que causaba a los vecinos esta empresa se han ido resolviendo en gran medida

por la labor de inspección y control seguida en estos dos años

y de funcionamiento necesarias para reducir sus emisiones por debajo de los índices marcados

que hicimos el pasado diciembre rebajando a la mitad los valores límites de la anterior

que no estamos haciendo nada y que estamos permitiendo irregularidades porque esta empresa sea de dueños del pnv

de venir a esta tribuna a decirme esto tan alegremente

me quedo a cuadros se han hecho más de treinta actuaciones entre requerimiento inspecciones y controles de la calidad del aire en las instalaciones en el entorno de zalla y güeñes

a las plataformas de vecinos y a esta cámara de hecho desde marzo no se han producido incidencias con esta empresa sabes cuáles son los valores de emisión de partículas en los últimos meses medidos en el opacímetro colocado en la propia chimenea en junio una media mensual de dieciocho microgramos por metro cúbico de aire cuando el límite es setenta y cinco en julio quince microgramos en agosto veintitrés

y que ahora vamos a realizar la misma campaña de control de calidad del aire en zalla

en el municipio lo he dicho muchas veces nuestra misión no es

que se cumplen los requisitos ambientales todos los días durante todo el año

y sin considerar los intereses que pueda estar en juego en la comarca en las próximas elecciones municipales

señor becerra no es serio y creo o por lo menos yo consideraba que usted tenía más seriedad en este

gracias presidenta señora consejera san josé señora

las reflexiones que tratamos de llevar desde nuestro grupo a esta cámara en relación con el desarrollo con la implementación con el fomento de la economía social pues va también el objeto de esta iniciativa de esta interpelación es un buen momento para dos cuestiones como

la interpelación por un lado para conocer el enfoque de su departamento en concreto de la dirección de economía social

en relación con los planteamientos realizados y aprobados en el debate monográfico que tuvimos sobre economía social sobre la comunicación del gobierno y por otro

igual más ambiciosos en este sentido el análisis de experiencias de fomento y apoyo a la economía social

estructura de la economía social pues también hemos visto referencias

lejos de nosotros donde podemos mirarnos desde luego la economía social probablemente sea un debate que pase bastante desapercibido en la sociedad en los medios de comunicación en la consideración

pero nosotros queremos seguir dándole la importancia que tiene porque es un elemento de futuro clave y además lo identificamos como tal clave en el desarrollo económico en el desarrollo del empleo

y lo hemos visto también recientemente en otra importante circunstancia

del uno al tres de octubre con la declaración de bilbao en relación con algunas cuestiones donde usted participó

y donde se ponen de manifiesto cuestiones muy relevantes en relación con la economía social

identificativo sobre todo en la economía social incluso

que promueva y que haga una resolución en relación con estas formas especiales y tan características de economía

el debate de la comisión de trabajo donde debatimos sobre economía social a partir de la comunicación del gobierno que también pidió este parlamento al principio de esta legislatura y también pues pues pudimos aprobar después de ese debate una serie

de cuatro de junio aprobó una serie de resoluciones

de diferentes y diversas características he puesto en la justificación dos de ellas

el parlamento vasco declara que la economía social y eso es porque hay que reconocerlo es un modelo enraizado en nuestro pueblo y en nuestra cultura y que es también expresión significativa y eficiente de diferentes valores y prácticas positivas actualmente vigentes que se recogen de forma adecuada

eso es un elemento una seña de identidad de las que podemos tener no podemos tener varias señas de identidad

histórico que ha tenido esta forma de desarrollo económico pero también decíamos entre otras cosas que el parlamento

a que incluya en los planes de fomento del emprendimiento líneas de trabajo herramientas de dotación económica para el impulso de emprendimientos basados en valores de naturaleza colectiva y social así como son la autogestión la democracia el trabajo en red la implicación

que son importantísimos y que son elementos de futuro en la creación de empleo y en el crecimiento económico

que tenemos aquí decíamos que como referencia debemos de observar con interés iniciativas además que se están poniendo en marcha en otras partes y que demuestran lo importante que para la creación del empleo

hacíamos mención y seguiremos hablando de ello a una experiencia que hemos visto como increíble prácticamente

es decir el pacto por la excelencia de la economía social alcanzado este año en la región de murcia

es un elemento que hay que conocer porque es un ejemplo impresionante

donde la economía social además tiene importante presencia de características distintas a la nuestra pero que hemos

cómo han apostado en esa comunidad de una manera impresionante ese pacto para la excelencia de la economía social en dos objetivos en la búsqueda de la calidad y la cohesión social y la referencia del empleo

diferentes ámbitos institucionales y especializados o profesionales o miembros de la economía social

que tiene sesenta y tantas medidas que aborda

seiscientos veintitrés proyectos y que tiene un objetivo crear empleo de calidad y cohesión social en esa región pero que

ámbito de actuación dos mil dieciocho dos mil veinte y que implementa cincuenta y dos millónes de euros fíjese usted en la región de murcia es decir en un pacto por la economía social

diferentes medidas diferentes estructuras de capacidad de actuación

documento es largo es interesante y ese sentido hemos visto

cincuenta y dos millónes de euros puedan ser empleados pero hemos visto la referencia algunas veces décimos que el país vasco espejo donde otros se pueden mirar nosotros podemos ser también o podemos ver otros espejos u otras referencias que nos interesan es decir estamos en un buen momento

esta interpelación tiene su objetivo vuelvo a repetir las tres cuestiones básicas el ejemplo que he puesto como qué planes puede haber en relación con el fomento o con el impulso de la economía social que tantas veces hemos pedido y que lo piden los grupos y los colectivos implicados

el debate de esas resoluciones y cómo las valoran desde su pues unos cuantos meses desde que antes del verano hicimos

instaban al gobierno a una serie de cuestiones y a ver como lo está enfocando y desde luego pues el planteamiento sobre economía social y las conclusiones del foro global de economía social celebrado en bilbao en

que todos pueden conocer porque ahí está efectivamente cuando hablamos

en el debate monográfico de la comisión de economía social nos referimos a un elemento fundamental

recogiendo esa inquietud en ese foro de economía social que fue el que vinieron mil setecientos personas que

gente de todo el mundo además a hablar de eso tenemos

de la economía social en la unión europea ese consejo de la unión europea de siete de diciembre

algo que tiene que ser de motor para las políticas públicas no que la economía social

diversos contextos nacionales y de bienestar social pero con valores y características y objetivos comunes combina actividades económicas sostenibles con un impacto social positivo ajustando el mismo tiempo los bienes y servicios a las necesidades y desempeña u papel importante bueno dice muchas más cuestiones que no me voy a referir pero yo creo

reflexionar sobre economía social muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

sobre los propósitos del gobierno vasco en las políticas de impulso y fomento de la economía social para los próximos años me consta que usted

de la economía social como lo demuestran las iniciativas con ellas relacionadas que asiduamente presenta en esta cámara precisamente en el primer semestre de este año usted ha señalado presenté en la comisión de trabajo y justicia una comunicación que contenía los planes de actuación de la dirección de economía social para el periodo dos mil diecisiete dos mil veinte

de los agentes más representativos y dinámicos de la economía social en euskadi para debatir sobre los principios de la economía social e incorporar sus aportaciones contamos con la colaboración entre otros agentes de asle

laborales de euskadi así como con varias empresas de sus asociadas del consejo superior de cooperativas de euskadi la confederación de cooperativas de euskadi y de todas las federaciones que la integran del ámbito cooperativo también contamos con la corporación mondragon y todas sus divisiones industrial distribución financiera y formativa del en representación de las empresas de trabajo asistido de gizatea por las empresas de inserción

alternativa y solidaria colaboraron en el trabajo las tres diputaciones forales los ayuntamientos de las tres capitales y eudel también participaron en el proceso de elaboración de los planos los cuatro sindicatos más representativos de euskadi y las tres universidades vascas

como puede observar señoría una amplia representación social e institucional con una relevancia especial de los sectores de la economía social vasca

y enriquecido por esas cincuenta y ocho propuestas de resolución que como ha señalado sus señorías aprobaron y creo que no exagero si defino a los planes de actuación de la dirección de economía social como un verdadero pacto vasco para el fomento la promoción la expansión y la difusión de la economía social

la apuesta por la economía social en euskadi tiene una dilatada y exitosa historia pero este gobierno ha querido apuntalar profundizar y reforzar esa tradición

hay un apartado completo dedicado a la economía social

reconocemos el valor de su iniciativa de impulso el plan cuenta con un apartado de definición de la economía social que como no puede ser de otra manera entronca perfectamente con los principios contenidos en la carta de principios de la economía social promovida por la confederación europea permanente de cooperativas mutualidades asociaciones y fundaciones y con las resoluciones de las instituciones europeas

además se diagnostica la situación de la economía social y se relaciona con los planes de otros departamentos o interdepartamentales del gobierno para coordinar acciones y para que las empresas de economía social puedan beneficiarse de las ayudas y apoyos contenidos en dichos planes como pueden ser

el de empleo joven el plan interinstitucional de emprendimiento o el de industrialización o la estrategia marco de industrialización dos mil veinte todos ellos dotados de presupuesto se han tenido en cuenta también los principales instrumentos de financiación impulsados por el gobierno vasco y las privados que existen en euskadi

de economía social impulsa la creación y consolidación de empresas de economía social pero estas acceden a todas las medidas de apoyo general del conjunto del gobierno

objetivos específicos que conllevan líneas concretas de actuación en diferentes ámbitos para su consecución todas ellas reflejadas en el proyecto de presupuestos que les presenté

las resoluciones que ustedes aprobaron a raíz de la comunicación que he aludido antes el proyecto de presupuestos de la dirección de economía social para el dos mil diecinueve contiene un presupuesto operativo con un incremento del dos coma siete por ciento con respecto al ejercicio dos mil dieciocho nuestra voluntad es continuar

comenzando en esta legislatura y queremos que permanezca en los futuros ejercicios vamos a continuar con las líneas de ayudas que venimos convocando desde hace años

estas son emprender en economía social y para la promoción territorial planificada de empresas de economía social para la incorporación de

para la asistencia técnica en las empresas de economía social las dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social para la formación en economía social y para la intercooperación empresarial en la economía social

en marcha importantes iniciativas en el fomento de la economía social

responsabilidad social empresarial y participación de las personas trabajadoras en empresas de economía social para el próximo ejercicio proponemos el incremento referido

los nuevos programas creados la apuesta decidida por esta política de fomento se evidencia en el incremento de las partidas comprometidas para el dos mil veinte que ayudarán definitivamente a asentar las líneas subvencionales propuestas por el gobierno para la presente legislatura

dos mil diecinueve muchos de ellos continuación de los emprendidos en el año dos mil dieciocho

un relato de la transformación de la sociedad por medio de la economía social que cuenta con cuatro ejes el económico empresarial

el medio ambiental y el eje común el de las personas el segundo proyecto es el de establecer los indicadores necesarios para medir los principales parámetros de la economía social el tercero es el proyecto denominado currículum educativo vasco que tiene por objeto

es decir elaborar material didáctico de la economía social

de empresas de economía social en el que están implicados junto con la dirección de economía social formación profesional y la universidad de mondragon

para cumplir con otra de las iniciativas contenidas en los planes de actuación de la dirección de economía social dos mil diecisiete dos mil veinte vamos a convocar un concurso para contratar un plan de comunicación

otro compromiso adquirido es el de realizar un análisis de las actuaciones del gobierno vasco en materia de responsabilidad social empresarial que permita posteriormente la inclusión de las cláusulas sociales en las actuaciones de los diferentes departamentos del gobierno finalmente daremos continuidad

cuyo objetivo es la difusión y promoción de la cultura participativa teniendo en cuenta la proposición no de ley aprobada por

para la promoción de un modelo inclusivo participativo vasco de empresa

creo que estamos dando respuesta a las necesidades de la economía social vasca y pensamos que el trabajo en esta línea debe seguir siendo intenso y constante el valor de la economía social como vía de mejora social y de la calidad del empleo lo merece

gracias señora san josé por su respuesta sí que veo que

la actividad del debate y de las cincuenta y ocho resoluciones aprobadas

del departamento esas resoluciones efectivamente ya iremos comprobando

hay que ponerlo en marcha pero sí que es cierto que también tenemos todavía mucho camino que recorrer mucho camino que recorrer en el apoyo a la economía social

mucho camino que recorrer de planificación es decir por eso yo me refería

algo que hemos visto como un elemento de referencia algo que nos ha parecido un ejemplo de un plan de excelencia y desde luego

al que me he referido antes y ahora voy a dar algunas cifras de lo que se refería ese plan ha hablado usted de diferente proyectos y están bien seguramente podrán ser

propuestas de resolución nosotros la diversidad en relación con los objetivos y lo que

por un lado pero luego incentivos efectivamente a la formación a la creación de empresas al apoyo a los socios

a la participación a las políticas de la unión europea desde luego al apoyo directo a las empresas y eso desde luego todavía hay que es manifiestamente mejorable dentro de los presupuestos manifiestamente mejorable dentro de los presupuestos hay que darle un empujón

como tenemos los mimbres es decir lo que tenemos es que seguir siendo estratégicos en relación con lo que hay con la riqueza en relación con la economía social y con sus diferentes expresiones las cooperativas las sociedades laborales lo que más se ve pero bueno toda otra

de posibilidades de trabajo en economía social como ustedes conocen que está perfectamente definido y por eso por eso nosotros también estratégicamente hemos entendido que además de lo que puede ser en su momento el debate de la ley de cooperativas que está pendiente de traer a este parlamento tenemos que seguir actuando por eso pedimos esa comunicación y por eso nosotros queremos seguir dando pasos y efectivamente en los pasos

me refería al plan de excelencia de la región de murcia

dos mil dieciocho dos mil veinte hablaba de cincuenta y dos millónes de euros o sea hay que decir con una serie de medidas de objetivos de metas es decir

se concretaban y por eso yo pido que pueda haber algo así también vuelvo a decir con las características que tenemos y sabiendo que el esfuerzo que hemos hecho también es importante y que no hay que igual en otros sitios ha sido menor pero por ejemplo en las metas macroeconómicas

que se haga más todavía por la economía social en este país hablaba de incrementar en un veintitrés por ciento el número de personas empleados en la economía social

en iniciativas de inclusión social de aquí al dos mil veinte eso decía o

habrá que ver las características propias pero pone unos objetivos conseguir

o conseguir vuelvo a decir magnitudes es decir cuestiones concretas trabajo estratégico conseguir que cuarenta y cinco empresas del sector

es decir vuelvo a decir incrementar anualmente la creación de empresas de economía social en un

lo que supone doscientos cincuenta empresas de aquí al dos mil veinte es

trabajo habrá que valorarlo después un plan de trabajo con cincuenta y dos millónes de

señora consejera y es lo que propondremos de una manera absolutamente constructiva en nuestra moción

un plan de excelencia de la economía social también en este país vemos que hay referencias no son ni por mucho tendremos que verlas

características propias y yo creo que además tienen perfecto encaje todas esas

de los que usted ha hablado que efectivamente son absolutamente necesarios y convertirlos en una actuación estratégica desde luego puede ser muy potente y muy importante y también anunciarle que seguiremos enmendando al alza los presupuestos

no sabemos si se aprobarán los presupuestos pero nosotros vamos a enmendar esperemos que por lo menos nuestra enmienda

tengo que insistir señor barrio que nuestra política de

en euskadi está consolidada y desde luego concertada con el sector le he puesto varios ejemplos y otro es el anteproyecto de ley de cooperativas que se está elaborando y desde luego con amplio consenso en esta actividad no voy a desdeñar otras experiencias pero defiendo que nosotros tenemos un modelo de economía social una trayectoria desde luego impecable unos resultados magníficos y un futuro que puede hacer que logremos esa sociedad que ha hablado usted también

nos hemos marcado unos objetivos que definen y orientan nuestro particular pacto por la economía social también nosotros tenemos elementos o magnitudes que nos dicen que los proyectos o las líneas de ayuda que desde luego ponemos en marcha

empleo y están creando empleo de calidad fomentar y promover más y mejor economía social desde luego es nuestro objetivo por medio de crear y transformar y de crecer y consolidar contando siempre con la colaboración pública y privada que constituyen desde luego los pilares en los que se asienta nuestra actividad

y la muestra más evidente de ello es el peso indiscutible de las cooperativas de trabajo asociado y de las sociedades laborales en nuestra comunidad

y de las consiguientes resoluciones de las instituciones europeas sin duda seguiremos participando en todos los foros españoles y europeos que tengan por

nuestro modelo se relaciona con el impulso de la responsabilidad social empresarial competencia que asumimos y que abarca un nivel superior al de la economía social

había además varias que nos instaban a tener en cuenta esta dimensión en el primer semestre del próximo año esperamos crear también un foro interinstitucional con las diputaciones y ayuntamientos para coordinar las políticas

empresarial fruto de la concertación de estas iniciativas públicas y privadas en este parlamento aprobaron por unanimidad una proposición que nos instaba a promover un modelo vasco inclusivo participativo de los trabajadores en las empresas las actuaciones que queremos emprender en el próximo ejercicio

presupuestaria para su difusión y promoción y desde luego que cojo el testigo de esas enmiendas que ustedes van a hacer para el fomento y la promoción

el panorama que nos ofrece en el futuro señor barrio desde el punto de vista del trabajo y su dimensión social

es que la economía social ofrece un paradigma donde la inclusión la participación y el crecimiento justo y sostenible van de la mano estamos de acuerdo en potenciarla en euskadi tenemos una experiencia y realidad ejemplar sinceramente señor nuestro modelo creo que no es para cuestionarlo sino para fortalecerlo y reafirmarlo contamos con los instrumentos adecuados con la experiencia y voluntad de los agentes implicados

líneas de trabajo y actuaciones que pretenden un futuro más igualitario sostenible y responsable que pongan a las personas en el lugar preferente de la actividad social

son una herramienta esencial para lograr este objetivo eskerrik asko

señora otamendi solicita en la formulación de su pregunta cambios

cuestiona usted la labor que desempeña osalan y pretende que cambie su modo de trabajo radicalmente

rebatirle de manera rotunda la valoración que hace sobre el trabajo que desempeña osalan pues este organismo autónomo cumple estrictamente con las veintitrés funciones que le asigna la ley concretamente la siete barra noventa y tres de veintiuno de diciembre

y empresaria respecto a la seguridad y salud de las personas que trabajan en su empresa por lo tanto son su responsabilidad las actividades de prevención de riesgos laborales bien con recursos propios

no obstante el empresario debe establecer los mecanismos oportunos para integrar a los trabajadores y trabajadoras en la gestión de la prevención de los riesgos laborales en este contexto es muy relevante

los agentes sociales osalan por su parte cumple básicamente un papel de asesoramiento previo a la determinación de los riesgos laborales de cada actividad de análisis y preparación de las correspondientes guías de prevención de riesgos laborales de control de que se están cumpliendo las medidas determinadas y con la obligación de comunicar a la autoridad laboral los casos de contravención por parte de las empresas o las personas a su cargo de las normas de prevención de riesgos laborales pero además los ciento setenta y dos profesionales que componen la plantilla de osalan desarrollan una intensa actividad para distensión de la cultura preventiva como ha señalado en el conjunto de la sociedad

capacitación reconocida señora otamendi toda esta labor se hace en función de la normativa vigente pero también de la planificación y análisis y la concertación en el seno general del consejo general de osalan elemento de referencia es la estrategia vasca de seguridad y salud en el trabajo pero como ya conocen ustedes cada año se elabora un plan de gestión que determina las acciones concretas a llevar a cabo por supuesto que lamento cada accidente laboral y con más pesar si este

tenga la seguridad de que se analiza cada uno con la pretensión de prevenir para que no vuelvan a ocurrir y la transparencia es nuestra norma de actuación y por eso no ocultamos los datos sino que los tenemos presentes para obligarnos a mejorar nuestra labor

perfectamente válida y contrastada que vamos a seguir desarrollando y que lo hacemos cada año y que vamos a continuar con medidas que

en el proyecto de presupuestos que les presenté hay varias novedades directamente con la extensión de la cultura preventiva también se contempla el incremento de tres nuevos técnicos de prevención de riesgos laborales a los que queremos sumar otros tres en lo que queda de legislatura

dirigida a la lucha contra la siniestralidad en el sector primario y maderero

a la formación no solo de delegados y delegadas de prevención sino a fomentar la cultura preventiva en los y las jóvenes de educación primaria y formación profesional señora otamendi para implementar todas estas medidas

generales de esta comunidad y que todos los agentes que tienen nombrados representantes en el consejo general de osalan participen en él eskerrik asko eskerrik asko

señora etxebarrieta del departamento de trabajo y justicia hará todo lo posible dentro de sus competencias para controlar las actividades

se sujetan a la ley el instrumento que tenemos para realizar ese control y para emitir informes o de requerimientos a las empresas investigadas es la inspección de trabajo transferida a la comunidad autónoma

en el anterior pleno de control las actuaciones del sistema de inspección de trabajo y seguridad social a efectos de una adecuada planificación por las dos administraciones titulares del servicio se ha estructurado en torno a cuatro grandes ámbitos materiales de intervención

y empleo competencias de la comunidad autónoma de euskadi y seguridad social y economía irregular que son competencia de la administración general del estado la inspección sobre la que tenemos

durante el año dos mil diecisiete se realizaron once actuaciones que dieron lugar a cuatro infracciones y tres requerimientos en este año dos mil dieciocho se han realizado ya doce actuaciones

de que contra la empresa que usted alude se presentó una denuncia el veintiséis de septiembre

poder darle más datos por el deber de sigilo que obliga a los inspectores e inspectoras el artículo diez de la ley ordenadora de la inspección de trabajo

que el expediente está gestionado por la inspección de trabajo no transferida tengo que decirle que entre las dos existe coordinación pero no trasvase de expedientes cuyo contenido no conocemos hasta que se resuelvan

por otra parte decirle que tanto la autorización como el registro de las agencias de colaboración corresponde en nuestra comunidad autónoma a lanbide

auzolanaren definizio berezia zuek duzuena ni diagnóstico de la situación ni decisión sobre dejar de discriminar a las trabajadoras del hogar ni tampoco proceso de participación ni documento para prevenir los accidentes laborales en breve lo tendremos erantzun diguzu mila aldiz

el problema es que de mientras mientras esperamos a ese breve las trabajadoras del hogar siguen sin permisos de conciliación discriminadas por la administración

primera intervención y además con respecto a las cuestiones que usted ha planteado desde luego estamos trabajando en ellas y próximamente vamos a traer al parlamento

se aprobaron en la pregunta que desde luego me ha hecho usted subyace

que se nos encajona en los sectores productivos menos valorados y peor pagados es una realidad que la parcialidad no deseada y la temporalidad

todos y todas ustedes aprobaron esas iniciativas que desde luego cumpliremos y traeremos aquí al parlamento y para el gobierno se ha convertido en un objetivo

romper con esa brecha salarial por eso hemos incorporado al presupuesto importantes

ese objetivo no cabe duda de que el sector de las empleadas del hogar

esa situación además de las labores de inspección se encuentran con dificultades para llevar a cabo su actuación ya lo hemos señalado aquí en otras ocasiones estamos hablando

se desarrolla en el domicilio del empleador y este es inviolable por lo tanto

desde luego la denuncia tiene que ser la forma en la que nosotros tengamos conocimiento de estas situaciones fraudulentas es que no puede ser otra la denuncia formal o la denuncia a través de las medidas que hemos incorporado que es el buzón del fraude a través de la dirección de trabajo y seguridad social porque
yo animo a todas y a todos a denunciar situaciones de fraude y desde luego a colaborar con las instituciones bien con la inspección de trabajo la fiscalía o lanbide eskerrik asko sailburu andrea